ángel toña se incorpora a un gobierno en marcha y he tenido en cuenta su capacidad de integración y conformación de equipos también su compromiso con la economía productiva

de empresa como un reto compartido para las personas propietarias directivas y trabajadoras he apreciado su independencia y compromiso social

tiene una experiencia profesional acreditada y es una persona comprometida con los principios y valores que inspiran el ideario de este gobierno la única pretensión de su grupo

desde el mismo lunes desgastar desprestigiar a la persona desprestigiar al gobierno la nuestra va a seguir siendo reforzar el compromiso ético y con el buen gobierno

behar bezala erantzuteko zentzuz eta zintzo ha hablado usted de su

y se quiere usted central en una cuestión puntual bien ha ido ganando día a día la confianza personal y profesional de todo su entorno su inmediata reacción informando y poniéndose a disposición

un respaldo tan inmediato y unánime del conjunto de sindicatos vascos de los representantes de los trabajadores de todos los trabajadores

me ha llamado poderosamente la atención la valoración que inicialmente han manifestado ustedes pensaba que ustedes iban a reconsiderar su posición inicial sin tener la deferencia de escuchar las aclaraciones del propio consejero
sería más coherente señor maeztu que reconsideraran su posición eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

zuri zuzenduta dago creo que me responderá usted creo que entonces es su estreno en esta tribuna

el lehendakari a propósito de otra intervención a lo largo de esta mañana que nunca desoye un mandato en este parlamento

un acuerdo parlamentario gobernu honek berriro bertan behera utzi du legebiltzarreko akordio bat se ha incumplido el acuerdo de fecha de catorce de junio de dos mil catorce de publicar en el mes de enero la orden del consejero de empleo y asuntos sociales por la que se establecen las cuantías máximas de los gastos específicos

no hay justificación para retrasar el pago de estas ayudas e incumplir el mandato del parlamento son ayudas puntuales

la calefacción el agua por eso queremos saber desde el grupo popular qué criterio le ha llevado al gobierno a incumplir

señora garrido el departamento no ha podido como le había pedido este parlamento y como era su deseo aprobar la orden de las ayudas de emergencia social en el mes de enero nuestra previsión de todos modos es poder presentarlo para su aprobación este mismo mes de febrero

todo lo posible pero hay cuatro trámites previos que es difícil encajar en un solo mes

es preciso conocer si se produce alguna modificación en el salario mínimo interprofesional porque las cuantías se calculan en función de él

en tercer lugar hay que someterlo a la comisión interinstitucional para la inclusión social y finalmente hay que someterlo a la oficina de control económico

señora garrido y lo siento yo también han impedido publicar la orden en el mes de enero pero los plazos se han acortado sensiblemente con respecto al año anterior
cuando se publicaron en abril eskerrik asko toña jauna

señor lehendakari por lo tanto este parlamento ahí me ciño a las palabras del consejero del nuevo consejero

parlamento desde luego no ha sido diligente en el cumplimiento de un acuerdo parlamentario que es de fecha de catorce de junio de dos mil catorce no se pueden consentir más demoras

para sufragar necesidades urgentes y sobrevenidas basta ya por lo tanto de incumplimientos y la prioridad de este gobierno está claro que no son las personas que lo están pasando peor este dinero es básico para familias que están atravesando una situación de escasez económica este gobierno tiene que garantizar que el sistema de protección llegue a los que realmente lo necesitan y que el sistema estén con los que lo tienen que estar

lamentablemente este gobierno no está con los problemas reales de los ciudadanos y lo hemos visto en este incumplimiento

la inacción de este gobierno en esta materia está claramente ocasionando un perjuicio a las familias por lo tanto señores del gobierno póngase manos

señor consejero tiene usted varios deberes con este parlamento primero cumplir

ha reconocido expresamente que el mandato parlamentario en relación a la orden de las aes incumplido corregir de una vez por todas la ineficaz gestión de lanbide las ineficiencias detectadas y que lanbide realmente cumpla los objetivos de empleabilidad que tiene

en función de la legislación vigente y poner fin a las situaciones irregulares y de fraudes que las hay y estamos conociendo lamentablemente también todos los días relación a esta cuestión cuestiones que son sangrantes

esas irregularidades que están ahí y explicar también cómo no consejero cuáles son por lo tanto las medidas que va a adoptar en relación este importante

tiene la responsabilidad de dirigir y como no también explicar las noticias en relación que han aparecido a su persona

justo el día después de su nombramiento esperemos que dé cumplida respuesta a todas estas cuestiones con celeridad en una comparecencia que desde luego este grupo va a solicitar en

el veintitrés de diciembre señora garrido se aprobó el presupuesto en este parlamento en el que usted estuvo y el incremento del salario mínimo interprofesional se publicó

sin esos datos cualquier ejercicio previo de asignación de recursos a los ayuntamientos y de establecimiento de cuantías habría sido incorrecto y habría sido necesario corregirlo

ha seguido su curso administrativo el más rápido posible la comisión interinstitucional para la inclusión social se celebró el veintitrés de enero

estos son los tiempos que requiere su tramitación en todo caso dado que los fundamentos de la orden para dos mil quince no sufren variación

por lo tanto antes del treinta y uno de enero la directora de servicios sociales remitió una circular informativa a todos los servicios sociales de las entidades gestoras

que incluía entre otros aspectos la asignación presupuestaria provisional así como la aclaración inicial de tal provisionalidad

sobre la oportunidad de avanzar en la gestión de las solicitudes o dejarlas a la espera de la aprobación de la orden con el criterio que ellos estimen oportuno y en relación con la segunda cuestión que usted señora garrido y otros parlamentarios de este parlamento han sacado no tenga usted ninguna duda que en el momento en el que se me requiera o que yo pueda hacerlo yo cumplida explicación de todo lo que ha podido suceder y todo lo que yo pueda conocer y por supuesto ustedes tendrán la última palabra

se han producido tres incrementos el primer incremento fue aprobado en noviembre de dos mil siete el segundo incremento fue aprobado en noviembre de dos mil ocho

en consecuencia se han aprobado subidas de cuotas en los cuatro mandatos que preceden a este sin embargo este gobierno consciente de la situación económica que actualmente viven algunas familias

de modo que siguen vigentes las cuotas aprobadas en dos mil once cabe añadir que mientras la cuota media de las haurreskolak ha subido un quince por ciento desde el dos mil tres el ipc ha subido un veintiséis por ciento

así mismo si analizamos las cuotas vigentes en el estado para la etapa cero dos años podemos observar que las del consorcio haurreskolak están perfectamente alineadas con la tendencia actual

barcelona madrid y euskadi para un servicio asistencial de ocho horas con comedor para hacer una comparativa

en gijón de trescientos veintisiete euros en barcelona doscientos setenta y tres euros

y en euskadi de doscientos ochenta y ocho euros también es importante señalar que muchos de los casos no se realizan diferenciación alguna de cuotas en función de los horarios este hecho hace que la cuota de las familias que solo necesiten hacer uso del servicio durante media jornada

se vea considerablemente incrementada en nuestro caso se establecen cuotas en función del número de horas de servicio además este hecho resulta de gran importancia dado que en la comunidad autónoma de euskadi

son inferiores a la media estatal así mismo tampoco podemos olvidar que el gobierno vasco ofrece becas para las familias que utilizan el servicio del consorcio haurreskolak

durante el curso dos mil trece dos mil catorce se concedieron becas a trescientos sesenta familias que hacen uso del servicio haurreskolak lo que supone el ocho por ciento del total quiero subrayar que ninguna sola familia de las que ha solicitado la beca

es decir se han otorgado todas las becas solicitadas por las familias en cuanto a la cuantía media de las becas es de novecientos euros por niño en consecuencia puedo afirmar con rotundidad que este gobierno ha realizado una apuesta clara

por ofrecer en la primera etapa de educación infantil un servicio de máxima calidad y accesible a la mayoría de las familias a pesar de no ser una etapa de escolarización obligatoria

en mayo del pasado año tuvimos ocasión de presentar nuestro punto de vista en torno al sistema de matriculación del consorcio haurreskolak fue entonces cuando anunciamos nuestro compromiso de analizar la posibilidad de revisar el tema actual de cuotas

esta medida la que venimos trabajando desde entonces tiene su origen no en la bajada del número de matriculaciones

sino en la necesidad de adecuarnos a la realidad socioeconómica actual de las familias quisiera realizar también una puntualización al respecto

que dicho descenso está motivado por el actual sistema de matriculación y especialmente por las cuotas que asumen las familias con su permiso voy a aprovechar esta ocasión para desmentir dicho vínculo causa efecto egia da matrikulazioa jaitsi egin dela azken urteotan

que establecen cuotas diferentes en función de la renta per cápita de los miembros de la unidad familiar ikus dezakezuenez herrialde gehien gehienetan zero bi arteko haurren kuotak ezartzerakoan

así como la proposición no de ley aprobada en junio si queremos adoptar la mejor de las soluciones aquella que mejor se adopte a nuestra realidad sociodemográfica y económica actual

ese es precisamente el trabajo que estamos realizando en la actualidad y que esperamos tener concluido en breve de este modo es intención de este departamento realizar próximamente nuestra propuesta de adecuación de sistema de cuotas del consorcio haureskolak en función de los ingresos familiares de cara al curso dos mil quince dos mil dieciséis

gracias señora presidenta buenos días a todos seguimos hablando de etb señora consejera

hoy como he pedido su interpelación o le he interpelado aquí pues no tiene más remedio que contestarme lo digo porque la última vez

pues al final se trajo la directora de e i te be y usted explicaciones

la semana pasada en este pleno la mayoría parlamentaria pidió al gobierno el cese de la directora general de e i te be

intervención nos centramos fundamentalmente en una de ellas porque no queríamos desviar la atención pero eso no quiere decir que no haya otras razones por las que hayamos pedido la dimisión de la directora

voy a hacer la referencia a todas ellas que son de sobra conocidas porque en otras ocasiones ya lo hemos hecho decía en este pleno de la semana pasada que e i te be

y su equipo el peor momento de su historia dirección y plantilla enfrentadas redacciones empapeladas de denuncias audiencias de televisión que no despegan y una gestión laboral a todas luces desastrosa y la primera huelga general que ha

general la verdad es que debería de ser vergonzoso aunque parece que no lo es

protestando por la vulneración de los derechos porque aunque la oferta de empleo público fuera justificada como una regularización de los derechos

la inspección de trabajo ya había dicho que eran trabajadores del ente porque formaban parte de la plantilla

una oferta de empleo público que lo pusimos de manifiesto desde el principio era todo lo contrario a una oferta de empleo público era una destrucción de empleo por mucho que se quisiera vender y lo digo así vender como una creación de empleo

a la justicia y también en la justicia está la propia oferta de empleo público impugnada por la abogacía del estado

qué va a pasar si dentro de unos meses un juez acaba tumbando el ere

a reintegrarse a que sean readmitidos y a que cobren sus sueldos qué se va a hacer entonces quién va a asumir responsabilidades

qué va a pasar entonces se va a hacer otro ere desde el principio nosotros dijimos que esa oferta de empleo público

acabó siendo un ere descubierto pero una vez más en esa utilización del lenguaje ahora se dice que es un ere instrumental sí instrumental es es el instrumento para echar a la calle a unas personas que tienen una relación laboral con el ente

lo que supone es que setenta y nueve personas que son empleados de e i te be gracias a ese ere dejen de serlo ese es el ere instrumental y han acudido al eslabón más fácil como he dicho en muchas

se habla de sostenibilidad de etb se habla de racionalización

todos los gastos en productoras por qué no se hace un estudio en profundidad porque en esa comparecencia en la que me he referido yo le pregunté si se podía hacer la radio con menos personal y con la misma calidad que ahora y si es así

secciones del ente o se van acudir a productoras para seguir haciendo la radio como se está haciendo en este momento y a qué productoras se va a acudir como decía una nefasta gestión que ha sido censurada por esta cámara y por los propios porque no solo desde aquí hemos pedido la dimisión también los trabajadores del ente han pedido la dimisión de la directora de e i te be también nosotros pedimos la dimisión y también es algo al que hemos hecho referencia en otras ocasiones por la dirección que lleva el ente por los contenidos que tienen

estos contenidos se reducen fundamentalmente a la agenda de los grupos nacionalistas del partido nacionalista vasco del gobierno y de bildu de esta manera

el nuevo modelo del estado el acuerdo bilateral con madrid los presos de eta son objeto de debate mañana tarde y noche en todos los programas de la televisión pública vasca las iniciativas del partido nacionalista vasco o de bildu

son la referencia obligada eso sí las de otros grupos de la oposición o aparecen siempre en las colas de los informativos o no aparecen o si aparecen los programas de debate

siempre nunca para nada que resulte favorable para los grupos no nacionalistas y dije y lo mantengo

es real y ese divorcio se plasma en las audiencias cada vez más bajas porque la visión sectaria y los intereses partidistas

suplantado a las preocupaciones reales de los vascos en los contenidos de los informativos y en los debates

lo que le preocupa a los ciudadanos es el empleo la recuperación económica y le preocupa que no haya escándalos y por supuesto los escándalos de aquí no aparecen nunca las comisiones de investigación de este parlamento

a los ciudadanos les preocupa en un índice muy inferior lo que es la agenda diaria de e i te be es importante que en una cadena pública todos los vascos todos los ciudadanos con independencia de su ideología se sientan reflejados

y porque no es posible que solamente algunos se sientan representados que algunos espectadores sean espectadores de primera categoría y otros sean espectadores de segunda categoría la prioridad en los contenidos y en el enfoque de e i te be

sino de oportunidad pero de oportunidad política y de oportunidad política siempre de los mismos de los nacionalistas porque está haciendo absoluta en su labor de informar para pasar a adoctrinar y eso no es posible porque una televisión con el dinero de todos los vascos no puede ser una televisión de nacionalistas para nacionalistas porque como he dicho en otras ocasiones aquí quien lo paga

nacionalistas la verdad es que no hace falta esperar

presenten su nuevo modelo de estatus político si no tenemos más que ver e i te be ese su nuevo modelo de estatus político en el que solo tienen cabida los nacionalistas los no nacionalistas no cabemos en ese modelo y también le hemos pedido por el tratamiento del terrorismo del que hemos hablado ya

esta mañana en esta cámara aquí se oscila entre

y la complicidad nos encontramos que la contribución que hace e i te be para hacer realidad un relato sobre el terrorismo en el que la memoria sea una herramienta

es una contribución que no deslegitima el terrorismo

es una contribución desde la memoria absolutamente selectiva

por igual desde e i te be se busca cualquier aniversario para justificar la emisión de una película la producción de una semana de programación de e i te be la intervención de los familiares cuando se trata de los asesinatos del gal

no diceque no tengan que ser tratados en absoluto pero esos aniversarios no existen con las víctimas de eta que fueron muchísimas más que las víctimas del gal se dedican una semana entera a programas de lasa y zabala

la fuimos viendo en etb sin embargo aquí no con las víctimas de eta aquí eso no sucede en etb eso no sucede y su tratamiento

mostrar la cara humana de un terrorista pero películas como la de mil novecientos ochenta de no se puede emitir porque en palabras de la directora es sectaria eso es deslegitimación del terrorismo eso es una contribución

paso y luego me referiré más profundamente a lo que ya hemos hablado aquí a determinados tertulianos pero solo le quiero preguntar
qué va a hacer el gobierno eskerrik asko llanos andrea

respondiendo a la pregunta concreta que usted me traslada en su enunciado el propósito con respecto a la directora general de e i te be tal y como ya se ha comentado

por varias cuestiones que voy a mencionar en los próximos minutos y porque debemos actuar con responsabilidad critican pero no proponen la alternativa real es seguir apoyando como hasta ahora la labor de dirección de e i te be

permítame que antes de cualquier otra consideración plantee ante esta cámara una serie de reflexiones que considero son de interés no sea que el árbol no nos deje ver el conjunto del bosque en la justificación presentada en relación a esta interpelación habla de conflictividad laboral de bajas audiencias de la línea ideológica

entre otros asuntos además para aderezar esta mescolanza la presidenta de su partido la señora quiroga

es curioso realmente curioso señora llanos que dicho lo dicho

su grupo parlamentario coincida con su voto con grupos parlamentarios tan dispares como el grupo socialista upyd o euskal herria bildu

talde mistoa izan ezik como tantas veces se ha recordado últimamente ese día el consejo de administración de e i te be esto es su máximo órgano de decisión

con la consiguiente regularización de la plantilla una vez más

en dicho consejo están representados todos los grupos parlamentario a excepción del grupo mixto bien

y leo literalmente el consejo de administración autoriza a la dirección general a realizar una convocatoria pública de empleo para

con el fin de cubrir de forma definitiva cuarenta y nueve plazas fijas

para garantizar las necesidades actuales y futuras del proceso productivo

en el marco del proceso de regularización de los indefinidos no fijos se recogía por tanto regularizar cuarenta y nueve empleos y amortizar

setenta por ciento a favor con el apoyo de los consejeros propuestos por el pnv

aunque ahora parecen decir que no sabían lo que habían firmado y lab entre otros y que no se escude nadie en que en ese texto no se recogía un expediente de regularización de empleo como tal ya sabemos que ello se debe a un imperativo jurídico

posterior al acuerdo del consejo de administración solo ustedes el pp votaron en contra de dicho documento es así de veinte votos tan solo dos votos en contra creo que conviene recordarlo por tanto el ente e i te be tomó una decisión y la dirección

lehen aipatutako interesak tarteko a esa dirección le corresponden otras funciones entre ellas hacer frente a la difícil coyuntura que en general viven los medios de comunicación

es en términos sectoriales por detrás del de la construcción el segundo sector que mayor impacto ha sufrido por efecto de la recesión económica iniciada en dos mil siete

los medios de comunicación no han vivido en su historia reciente un periodo de mayor convulsión

e i te be cuenta bajo mi opinión y la de este gobierno un experimentado equipo profesional un equipo que gestiona con un descenso de su asignación presupuestaria una oferta informativa y de entretenimiento de calidad que la sociedad vasca viene demandando eitbren zuzendaritzak soslai profesionala du

porque el pp es el principal actor del descalabro del sector audiovisual los datos de audiencia de e i te be son muy satisfactorios en televisión ha cerrado dos mil catorce con el trece por ciento de audiencia en segunda posición en forta y con el mejor comportamiento sobre dos mil trece en radio e i te be radio tuvo en dos mil catorce

es el primer grupo de radio de la comunidad autónoma vasca en internet ha alcanzado

sobre dos mil trece e i te be es líder en audiencia de informativos también la radio generalista de e i te be

el liderazgo de los programas informativos y de actualidad de e i te be particularmente de radio y televisión están sustentados sobre todo por su profesionalidad

con una presencia equilibrada de las sensibilidades políticas en los distintos programas eskerrik asko uriarte andrea llanos andrea zurea da hitza

de que coincidimos en votos partidos distintos y que por eso

se ha utilizado en esta cámara y en otras cámaras en muchísimas ocasiones los motivos para votar lo que se votó aquí la semana pasada

pueden ser diferentes pero lo cierto es

y los trabajadores de e i te be no apoyan a la dirección de e i te be ese es el resultado y le diré que hombre choca que algo que vale aquí

cada uno por unos motivos pero se pidió el cese de un diputado perdón y el partido nacionalista vasco

había que cesarlo o sea lo que vale allí aquí no vale y en esta misma cámara

a propósito de otro debate que el delegado de gobierno era insumiso porque no cumplía con esta cámara porque no cumplía los requerimientos de esta cámara pues ya no es el delegado del gobierno el gobierno vasco es insumiso con lo que se decide en esta cámara e incumple

insumiso que le da igual lo que aquí se diga le da exactamente igual porque lo que vale

que llevan a esa votación a cualquiera es el resultado de la votación que todos por mayoría solicitaron el cambio en la dirección de e i te be

sí una la gestión laboral que ha realizado nefasta porque dice que la responsabilidad es del consejo de administración sí se votó en el consejo de administración es verdad y también como ha dicho nosotros votamos que no desde el principio

alguien tuvo que llevar esa ope que se vendió como creación de empleo

formaba parte por errores de direcciones anteriores no por responsabilidad de los propios trabajadores

dinero al ente un ente que ya de por sí sus ingresos se ven mermados y las audiencias también porque somos líderes en informativos pero oiga que nos pasan las audiencias todos los días eso sí nos dicen se cumplen los parámetros hombre no hace falta más que bajar los parámetros

y ya he cumplido no me haga trampas porque en el resto de las audiencias

se van perdiendo y claro que es una televisión de nacionalistas para nacionalistas si es que eso vamos creo que es algo tan

ni más discusión y que hay un tratamiento equilibrado oiga de verdad no hay un tratamiento equilibrado en absoluto que se da minutos a todos los partidos políticos sí para qué a cada partido político dependiendo de si es de un espectro o de otro también

muy diferente porque en unos es o para ensalzar el derecho a decidir

el pim pam pum siempre y ya se lo dije una vez para eso se pueden quedar con los minutos que le corresponden al partido popular y luego ya está el tratamiento

las preguntas son más acotadas pero el señor zubimendi que es que lo vendieron como un periodista de gara que no que fue un terrorista y que se encargó de ensalzar a terroristas y que dijo de gregorio ordóñez que

que de aldaya dijo que toda la sociedad lo que pensaba es que tenía que pagar y punto y ustedes vienen a decir aquí que no son responsables de que

y tenemos que oír en el consejo de administración cuando esta parlamentaria preguntó que ya lo iba a mirar peroqué va a mirar qué tiene que mirar la dirección de e i te be

no tenía que haber dicho desde el minuto uno me parece mal que esté

lo tengo que mirar pues alguien de sí sí me lo contestó así lo tengo que mirar y está en el acta

o sea que también hay que ser responsables eta gobernu honek

que este gobierno no va a descabezar a e i te be sería una irresponsabilidad debemos garantizar un ente público con una dirección con experiencia y un conocimiento del medio una dirección que gestione con rigor y con independencia la trayectoria de e i te be y todo eso nos lo garantiza la actual dirección

mal que le pese se lo decía hace unos minutos exigen cambios pero no proponen nada no sé cuál es el escenario que le gustaría para e i te be

hoy más que nunca hay que avalar una buena gestión profesional y la necesidad de repensar también desde dentro de e i te be

en un entramado de medios de comunicación cada vez más complejo el gobierno vasco tiene una responsabilidad institucional de gestionar el derecho a la información y a disponer de una oferta pública en euskera y castellano de canales de televisión

todo ello tiene un carácter de servicio público esencial tan solo me gustaría señalar una cuestión para ir terminando el parlamento es la casa de la palabra

porque sigo sin entender que estemos discutiendo sobre esta cuestión sin haberle escuchado previamente a la aludida la directora general de e i te be pidió comparecer públicamente para analizar esta cuestión la comparecencia tenía una fecha asignada pero no ha interesado esperar a ese día hubiera pasado algo si este debate se hubiera realizado o atrasado unos días

no hubiera pasado absolutamente nada pero no interesaba el único objetivo de esta actuación ha sido la de intentar desgastar al gobierno a través de e i te be una vez más eskerrik asko uriarte

porque le preguntamos en marzo le interpelamos en octubre interpelación que no pudo sustanciarse

pues mire porque afecta a su conducta como consejero y a la conducta de sus equipos directivos una conducta

no coincide con las exigencias y valores del código ético y vamos a señalar en qué mire usted intervino paralizando la fase final de un tribunal que juzgaba

de dermatología usted impidió con esa intervención que el tribunal nombrara a uno de los dos aspirantes es verdad que ambos con meritos suficientes

y por lo tanto aspirante con expectativas legítimas a ser nombrado

usted sin causa ni competencia para ello intervino sabe como se le llama a eso conducta impropia e inadmisible

con eso supongo que no pretenderá dar ejemplo al resto del personal de su departamento de cómo se debe actuar cumpliendo el código ético de buena conducta y buen gobierno que hablamos de integridad y de excelencia en fin no le voy a relatar todo el contenido de la interpelación y anteriores preguntas

de hecho es tan consciente de su impropia e inadmisible conducta que ha tratado en sus respuestas al parlamento de eludir sus responsabilidades personales enmascarándolas en un entorno político cambio de gobierno prudencia y cautela

que esa no ha sido ni es nunca una razón que pudiera justificar su actuación

que ha mentido al parlamento en su respuesta de veintiocho de marzo

hombre tomó posesión el diecisiete y esta actuación la hizo el veintiuno ya llevaba unos días

incorporado y el día que usted intervino para paralizar los tribunales solo se estaba celebrando ese tribunal su llamada paralizando los tribunales

y por qué luego lo enmascara interviniendo en otros tribunales que no estaban constituidos y que por lo tanto no tenían afectación alguna y usted vuelve a mentir al parlamento en la respuesta de veintiocho de marzo y sabe en qué

que se le pidieron instrucciones al respecto pero quién le pidió instrucciones usted no da ningún nombre ningún responsable de departamento le pidió ni hay escrito alguno en el que se le pidieran instrucciones y sabemos

es falso porque en sede judicial también se le ha preguntado qué instrucciones tenía y usted no ha podido presentar ninguna instrucción escrita

que le envió la doctora perjudicada por su decisión naturalmente

de ninguna manera se puede alegar eso como causa para intervenir el escrito de la doctora por tanto la pregunta es cómo se puede adoptar esta decisión

sin asesoría jurídica y sin una petición escrita de nadie responsable

y luego cómo se puede tomar esta decisión y luego desentenderse de ella y no hacer nada no hacer seguimiento sin exigir nada como respuesta en realidad de eso de esta secuencia se desprende perfectamente que su intervención directa

los pasos siguientes ya lo haría el equipo usted ya había hecho lo necesario suspender el tribunal después ya vino

y la pregunta es a qué intereses respondía esta participación desde luego los intereses públicos no

su intervención no tenía motivación legal ni ética y fue absolutamente

usted sabe perfectamente lo que ocurrió y de lo que se trataba únicamente de lo que se trataba era de paralizar el tribunal a usted le pidieron una única actuación usted sabrá quién se lo pidió

el único que se estaba celebrando cuando usted hizo su llamada actuación que luego enmascaró paralizando otros tribunales que evidentemente no estaban constituidos ni reunidos y cuáles fueron las consecuencias de su intervención usted miente de nuevo cuando dice en sede judicial y parlamentaria en respuesta escrita que la suspensión en ningún caso tuvo carácter administrativo ni carácter jurídico sino que solo obedeció a esas razones de cautela de cambio de gobierno

de los procesos se desarrollaron con normalidad y dentro del ámbito competencial que cada organización

oiga si no tenía carácter administrativo qué tenía acaso carácter político pues peor me lo pone señor consejero

gobierno vasco metiendo mano e inmiscuyéndose en un proyecto selectivo

la siguiente consecuencia fue como hemos dicho ya actuación

es que se dictara después una resolución declarando desierta la convocatoria

y dice que después todos los actos se fueron desarrollando con normalidad claro su normalidad es decir

de selección sin su intervención el tribunal hubiera concluido sus actuaciones proponiendo como jefe de servicio

que era la doctora almeida y que de esta manera quedó eliminada

fíjese que efectos administrativos y jurídicos por cierto

sobre todo del aspecto del favoritismo para ver el cumplimiento usted tiene que darse cuenta que su intervención ha originado

almeida que tenía una expectativa y aspiración legítima a la jefatura de servicio de dermatología finalmente su intervención permitió

acto nombrar jefe de servicio al segundo candidato en méritos y capacidad

al segundo candidato sin respetar los principios de igualdad

porque amparándose de una supuesta urgencia y por la puerta de atrás ha sido nombrado jefe de servicio el segundo aspirante en méritos al puesto aunque de ser verdad la urgencia

justificaría que se hubiera hecho este nombramiento sin publicidad y sin atender a los principios de mérito y capacidad que hemos mencionado porque sabe usted cómo se ha hecho este nombramiento invirtiendo en la prioridad de méritos vulnerando la ley de igualdad de mujeres y hombres

porque sabe usted que para un hospital universitario es esencial la competencia y la preparación sabiendo que la doctora almeida era la única candidata del servicio que poseía el título de doctor esa no es la forma de actuar de un equipo directivo

que el hospital universitario cumpla los requisitos exigidos por la ley

los hospitales universitarios tienen regulados los requisitos para ser concertados con las universidades y estos requisitos están regulados en una ley

suscritos con la universidad obligan a dotar a los servicios

entre los cuadros médicos pocos doctores y en dermatología únicamente una doctora este nuevo nombramiento

cumplir sus requisitos para alcanzar la categoría de hospital universitario en fin

tiene una calificación sabe cómo se llama eso discriminación nepotismo

en definitiva violación de derechos termino mi intervención pidiéndole que dadas todas las intervenciones en este caso

y siguiendo por las del equipo directivo como

almeida al puesto del que nunca se le debió impedir su acceso eskerrik asko roncal andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

erantzunak ez direla hondatzen mire con fecha veintiocho de marzo ya respondía una pregunta formulada por usted sobre el proceso de selección de jefaturas

amistad con alguien o solo quiere sembrar dudas sobre el proyecto de unificación hospitalaria

nos tiene ya excesivamente acostumbrados a este tipo de intervenciones por lo tanto no le voy a entrar a los descalificativos

por otro lado se olvida usted de ratificar su última interpelación y tiene que contestarle por escrito ese es el motivo

desde el inicio de la legislaturaeste departamento y este gobierno se han volcado

para dotar a los alaveses y alavesas del hospital terciario puntero

se parece poco al que encontramos arabako ospitaleen proiektua pazientea kontuan hartuz pentsatu da araban

en relación al proceso concreto por el que se interesa quiero dejarle claro que la información que le proporcioné a este parlamento hace casi ya un año atendiendo a un requerimiento suyo fue exhaustiva

y por más que usted pregunte y pregunte que llevamos así toda la legislatura

cuáles son los criterios por los que se fundamenta la provisión de jefaturas

regula en su capítulo tercero el régimen de personal y es concretamente el artículo veintiocho donde se establece que el concurso constituirá el sistema ordinario de acceso a un puesto funcional

que cada convocatoria de concurso será pública podrán tomar parte en ella el personal fijo perteneciente a la categoría correspondiente doctor

repase usted la ley universitaria y determinará los puestos funcionales y los destinos objeto de cobertura así como

para su adjudicación sin perjuicio de los demás requisitos previstos en la normativa vigente exige pues publicidad y garantiza la equidad la ley de ordenación sanitaria de euskadi es complementada por el decreto ciento ochenta y seis barra dos mil cinco por el que se regulan

estos vienen identificados y caracterizados entre otros aspectos por el perfil profesional requerido

y los efectos retributivos también en el caso que nos ocupa la previsión de las jefaturas de servicio sanitarias dicho decreto determina también

en los términos establecidos en la ley de ordenación sanitaria a mayor abundamiento esta legislatura el director general ha publicado la instrucción

a baremos de méritos que observarse en las convocatorias para la previsión de puestos de jefe de servicio

busca la máxima transparencia señora roncal en cualquier proceso de selección porque la transparencia es una de las guías de este departamento de salud por todo ello la previsión de todas las jefaturas de servicio en osakidetza se realizan conforme a criterios de legalidad

que tanto le preocupa este consejero ni suspendió ninguna convocatoria ni dictó ningún acto de carácter administrativo de efectos jurídicos

los procesos de provisión en osakidetza se desarrollaron y se desarrollan

y dentro del ámbito competencial que cada organización de servicios tiene atribuida le guste o no aplazar

temporalmente las celebraciones de tribunales en los periodos de cambio de administración como usted muy bien ha dicho setenta y dos horas después

cuando solo tenía una secretaria para configurar el nuevo departamento de salud

lógica y basada en la prudencia que cualquiera puede entender eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna roncal andrea zurea da hitza

señor consejero qué atrevida es la ignorancia fíjese todo lo que usted ha dicho no corresponde ni ha sido ratificado por el juez porque mire tengo aquí una sentencia porque primero ha sido una vergüenza tener que

sus derechos pero es que el juez le da la razón a la doctora almeida y contradice exactamente todo lo que usted ha dicho que ha contado muchas cosas en general

pero nada de lo que ha pasado con el tribunal de dermatología y lo que ha ocurrido en el tribunal de dermatología es eso fíjese usted dice el juez que su actuación y la del resto de

han actuado como desviación de poder se denomina sabe usted qué es eso de desviación de poder no lo digo yo lo dice el juez en su sentencia

que consiste en el ejercicio por un órgano de la administración pública de sus competencias o potestades para fines u objetivos distintos de los que sirvieron de supuesto para otorgarle esa potestad

de régimen jurídico y procedimiento administrativo común

el juez es francamente severo en su sanción hacia la actuación de la administración a usted le corresponde el mérito de la paralización del acto administrativo y dice que ni siquiera por prudencia ni por cautela procede suspender ni paralizar y continua el juez criticando el resto de las actuaciones también la del tribunal por haber aceptado someterse a la presión

cuando estaba en la fase final no haber finalizado sus tareas

a continuación la del director gerente declarando desierta una plaza cuando no había sido propuesta del tribunal que estaba juzgando la convocatoria porque el gerente no se puede sacar de la manga una resolución

de una propuesta del tribunal calificador y eso lo saben todos los equipos jurídicos como consecuencia de sus actuaciones continua el juez

y finalmente el juez falla que estima el recurso impuesto por doña maría victoria almeida llamas contra la resolución mil trescientos sesenta y cuatro barra trece del director gerente del hua hoy cesado

para la provisión del puesto de jefe de servicio de dermatología y que se anula esa resolución por considerar no ajustada a derecho

y declaramos dice el juez que la recurrente doña maría victoria almeida llamas es la seleccionada por el tribunal y debe ser considerada su propuesta

por la autoridad que corresponda señor consejero aparte de las sanciones jurídicas que le hace el juez en esta sentencia lo que le pregunto yo tienen los trabajadores de osakidetza que ir a la justicia a defender sus derechos

correcta suya y de sus directivos un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas mire cumpla y haga cumplir los valores y principios del código ético

que esté afectada o que pueda levantar cualquier sospecha de favoritismo a determinadas personas o entidades públicas o privadas y en este caso huele tiene un tufo terrible a favoritismo porque el tribunal había valorado dos concursantes

con mayor mérito y capacidad y ustedes hacen todo lo posible por eliminar eso para nombrar al segundo candidato a qué les suena

vuelvo a decirle que exija cumpla y haga cumplir el código ético y sobre todo exija que se reponga a la doctora almeida que se le repare el daño causado

mire señora roncal en ningún caso me ha interpelado usted sobre ninguna sentencia

una institución de la que usted es parte de la mesa una sentencia

sabrá que no es firme porque cabe recurso de apelación por otro lado está muy bien

ya le voy a mandar por escrito todas las sentencias laborales en contra de osakidetza en el período anterior y en el anterior y en el anterior del anterior porque perfectos no somos le voy a volver a repetir lo que le he dicho en la primera intervención que creo que no me ha escuchado

temporalmente las celebraciones de procesos de selección en el cambio de la administración es una medida provisional y no supone ninguna alteración del marco normativo establecido para los procedimientos de selección ez da inoiz ere aldatu

de un recurso planteado por una trabajadora a una resolución de un director gerente del hua no cesado sino jubilado señora roncal

jubilado por edad usted que habla de mentir por declarar desierta una plaza de jefe de servicio de todas formas señora roncal

mire las elecciones autonómicas se celebraron el veintiuno de octubre de dos mil doce después de las elecciones en seis semanas

se convocaron ocho jefaturas sanitarias en el hua el treinta y uno de octubre cuatro el nueve de noviembre

la octava la de que usted me está hablando el veintisiete de noviembre

ni intervendrá en ningún tribunal ni en ningún proceso de previsión

actuó con una diligencia extrema en el final de la legislatura anterior intentando elevar un tema puramente de nivel contencioso una resolución de un gerente y no voy a entrar en ese juego y le voy a decir más la doctora almeida con la que trabajé mientras fui director médico de ese centro y a la cual contesté a una carta

personal me ofrece toda la estima y toda la capacitación

estamos para velar la salud de los vascos y las vascas para garantizar que osakidetza continúe siendo el servicio referente que es

pública accesible universal y de calidad

no voy a perder el objetivo lo siento yo no he venido para eso eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako

señor consejero vamos a ver si le seguimos distrayendo un poco

subordinadas como instrumento de financiación de las cooperativas mana de una ley aprobada en este parlamento la ley de cooperativas de mil novecientos noventa y tres y que fue modificada en el año dos mil en el artículo cincuenta y siete punto cinco de la ley

se consideran financiaciones subordinadas las recibidas por las cooperativas que a efectos de apelación de créditos se sitúan por detrás de todos los acreedores comunes

hasta la aprobación de la liquidación de la cooperativa por lo tanto y de conformidadcon este artículo la emisión de las aportaciones financieras subordinadas de fagor se realizó

a la aprobación de la liquidación de la cooperativa es decir que con la liquidación de fagor electrodomésticos debiera darse la amortización de las aportaciones financieras subordinadas

está defendiendo los intereses y derechos de las personas consumidoras titulares de las aportaciones financieras subordinadas de fagor tal y como recoge la ley

coincide que en esta fecha el titular del juzgado de lo mercantil número uno de san sebastián aprobaba del plan de liquidación definitivo de fagor electrodomésticos y edesa

hasta el día de hoy han pasado casi nueve meses y falta por definir aún la amortización de las aportaciones financieras subordinadas que la ley fija y vincula con la liquidación de la cooperativa los titulares de las aportaciones financieras subordinadas de fagor

además los bancos les siguen cobrando gastos de custodia de unos títulos cuyo valor es cero y que están suspendidos de cotización desde hace dos años por eso le preguntamos qué está haciendo el gobierno vasco en la defensa de las personas afectadas por las aportaciones financieras subordinadas de fagor

todo absolutamente todo lo que está en sus manos lo primero que hicimos lógicamente fue ponernos de inmediato en contacto con la administración concursal de fagor

para así conocer qué podían hacer como acreedores las personas afectadas inmediatamente después kontsumobide informó a todas estas personas de forma

así le diré también que como gobierno llevamos meses trabajando coordinadamente kontsumobide y la dirección de tributos a través del órgano de coordinación tributaria

que desde octubre del dos mil trece no cotizan y también estamos trabajando con las entidades bancarias un trabajo que ya ha dado algunos frutos

ha aprobado un tratamiento especial para estos casos y nos consta que las instituciones forales del resto de territorios caminan en la misma dirección

estamos vigilantes y activos desde el primer minuto del proceso en todos los frentes donde podemos actuar haciendo en cada momento lo que entendemos es lo mejor lo mejor por supuesto dentro de lo posible para los intereses de las personas afectadas

la emisión de aportaciones financieras subordinadas como instrumento de financiación de las cooperativas que fagor electrodomésticos entró en concurso de acreedores en octubre del dos mil trece y que entonces sus activos estaban valorados en ochocientos millónes de euros en abril del dos mil catorce la administración concursal valoró estos activos en doscientos setenta y cinco millónes

por treinta y ocho millónes de euros reconocerá señor consejero que el día cuatro de junio de dos mil catorce el juez un auto donde figura la aprobación del plan de liquidación de fagor que según la ley también a esa fecha se tenían que haber amortizado las aportaciones financieras subordinadas sin embargo nada de eso ha ocurrido señor consejero las aportaciones financieras de fagor

aunque su valor sea cero las entidades financieras siguen cobrando gastos de custodia y las personas afectadas siguen pagando por unos títulos que no valen nada

según usted lo que está en sus manos lo cierto señor consejero es que este parlamento legisló que fagor emitió las aportaciones financieras subordinadas por valor de ciento ochenta y cinco millónes de euros

mire nosotros también estamos a favor de que las entidades bancarias

a las personas propietarias de aportaciones financieras subordinadas de fagor pero es legal

como usted conoce pese a que estamos de acuerdo desde kontsumobide nos hemos puesto en contacto

de momento en ese ámbito sin éxito pero es que es legal desde el minuto uno hemos realizado un estrecho y exhaustivo seguimiento del proceso lo hemos hecho para poder informar con claridad y rigor a las personas afectadas lo hemos hecho para articular todas aquellas medidas

y en cualquier caso amortiguar el impacto del problema que comparto con usted

el problema de la quiebra de fagor y por supuesto tenga usted claro que no hemos bajado la guardia ni la vamos a bajar como hasta ahora seguiremos haciendo en cada momento

todo lo que esté en nuestra mano pero no debemos olvidarnos nos encontramos ante un caso

le guste a usted poco o nada y a mí con usted poco o nada pero está en manos de la administración concursal de fagor porque así lo ha determinado

así pues hemos hecho hacemos y seguiremos haciendo todo lo que está en nuestra mano hau da pertsonen eskubideak babestu eta posible diren

de nuevo a molestarle porque parece que el parlamento es para usted una distracción molesta

mire el cinco de febrero todos los sindicatos hicieron pública una denuncia

esta acusación hacía referencia a que aprovechando una visita del consejero de salud junto con el lehendakari al centro de vía crucis de biocruces el día anterior

representantes de los trabajadores protestaron contra las políticas de su departamento

esta versión ha sido desmentida por su departamento esta parlamentaria no estuvo presente y por lo tanto se atiene a las descripciones de ambas partes lo cierto es que tampoco

porque era en su contexto muy parecida a un momento de tensión del pasado mes de octubre reflejado por todos los medios de comunicación entre el lehendakari y representantes sindicales
de nuevo sanitarios que habían aprovechado a otro acto público para realizar su reivindicaciones isiltasuna mesedez esa es la razón por la que le pedimos aclaraciones

del que sí hubo testimonio gráfico mi grupo pidió aclaraciones al lehendakari que facilitados por nuestra iniciativa pudo disculparse públicamente en esta ocasión no quisiéramos que la inexistencia de testimonio gráfico y mediático pudiera ser una excusa

análogo por el contrario y sin prejuzgar porque solo tenemos dos versiones contrapuestas le preguntamos

actitud hacia los representantes sindicales que protestaban en cruces y que pueda requerir una disculpa eskerrik asko

sabe usted que es un placer tratar con usted especialmente fuera del arco parlamentario el cuatro de febrero no tuve ninguna actitud

que supuestamente protestaban en el actual santo hospital de cruces puesto que ese día no llegué a ser testigo de la supuesta protesta sindical ni yo ni el lehendakari ni ninguna de las personas que participamos en el acto

la protesta sindical si es que se produjo antes de cualquier otra consideración me gustaría dejar claro públicamente que siempre siempre he mostrado el máximo respeto por los trabajadores

cuando era directivo y cuando he sido trabajador de osakidetza y también

inor ez dezala dudarik izan horrela baita la labor sindical y la representación de los derechos de los trabajadores es una labor legítima

que este consejero y este gobierno en su conjunto siempre ha respetado y respetará el pasado cuatro de febrero concretamente en biocruces el lehendakari la consejera de educación política lingüística

tuvimos un interesante y muy satisfactorio encuentro

con los coordinadores de las siete áreas estratégicas que investigación

durante el cual los investigadores pudieron explicarnos sus proyectos

a un grupo de profesionales muy ilusionado y motivado por el refuerzo y el éxito que la acreditación de la que estoy seguro que usted se congratula por parte del instituto carlo tercero supone para biocruces y para los investigadores

digu también me gustaría puntualizar para que quede claro que no falté al respeto a ningún representante de los trabajadores eskerrik asko darpón jauna

efectivamente si usted no ha faltado el respeto a ningún trabajador lo acepto perfectamente no tengo ninguna duda de que así será y como usted sabe también me congratulo con usted con que biocruces

y pueda efectivamente desarrollarse como instituto de investigación yo no soy representante sindical

sustituir el marco de relaciones entre la administración y sus trabajadores

que este gobierno tiene un serio problema de diálogo con los representantes sindicales de los empleados públicos y no nos extraña que pueda ocurrir incidentes de este tipo

en el pasado y hasta el lehendakari pidió disculpas en una ocasión como le hemos recordado anteriormente

también ocurre esto en el área de salud si fuera un mero problema de relaciones laborales no nos preocuparía más allá de que un consejero pueda o no faltar al respeto o pueda perder los nervios en un momento determinado

lo que nos preocupa profundamente es lo que está ocurriendo con el deterioro de las relacioneslaborales porque no permite abordar ninguna reforma necesaria y esto afecta

de lo que usted sea capaz de encauzar con ellos con sus representantes dependerá la calidad del servicio al que tienen derecho los ciudadanos

como el consejero que deterioró una de las joyas de la corona del autogobierno vasco como es el sistema sanitario público que espero no ocurra se lo dijimos en el pleno de política general no pueden sorprenderse ustedes del grado de conflictividad alcanzado en el sector público no pueden hacerlo porque se lo han ido ganando a pulso se han ganado a pulso la desconfianza

en el sector sanitario por otra parte usted como conocedora del medio que lo es sabe que la conflictividad no ha venido solo en esta legislatura no ha venido solo en la anterior ni siquiera ha venido solo a partir

para mí sería y es la más importante tarea tratar de tener un acuerdo laboral con los trabajadores y no seguir prorrogando el acuerdo que viene negociado en el año dos mil seis pero reconocerá usted que las circunstancias con independencia de las mayores

de este humilde consejero no está en las situaciones excesivamente fáciles pero en cualquier caso sepa usted también que mi aspiración

ni por lo bueno ni por lo malo por otro lado y para finalizar no tenga usted dudas de mi consideración por los representantes sindicales y por el conjunto de los y las trabajadores

el lehendakari hablaba antes de su manera de hacer política del acuerdo al pacto

varios acuerdos en relación a la defensa de foronda no hay compromiso para cumplirlos no hay compromiso político por su parte para cumplirlos usted el veintiocho de enero se fotografió con ana pastor dice que solo para hablar en relación al tav que la reunión solo concernía al tav así

ni el sentido de dicha reunión ni tampoco de lo que habían hablado sonriendo ese día hicieron público un acuerdo para llegar a ese pacto es decir del cumplimiento de que en el dos mil diecinueve

de foronda que se suponía que podría ser otro tema a tratar y entendemos que podría haberlo sido en caso de que no estuviese en la agenda ustedes no dijeron nada el acuerdo parlamentario no hablo ni de pacto ayer una diputada del partido nacionalista vasco en madrid se quejaba de que fomento no iba a cumplir con su acuerdo de que en el dos mil diecinueve se tuviese el tav ya funcionando en la comunidad autónoma vasca madrid tampoco cumple ni los acuerdos

es que de su actitud en la actitud de su gobierno en relación a foronda demuestra varias cosas que ustedes se acuerdan y pactan con las constructoras y defienden sus intereses los del tav pero ustedes acuerdan en este parlamento

a sus trabajadores que foronda es estratégico no solo para araba sino también para euskal herria como uno de los aeropuertos más importantes de carga pero no cumplen el acuerdo ya no hablo ni del pacto

una vez más a madrid la culpa es de fomento la culpa ahora será de que vayan a privatizar aena la culpa siempre va a ser de otros su responsabilidad una vez más sigue sin estar encima de la mesa qué

de lo que usted nos viene a decir siempre de que es la responsabilidad de madrid y que ellos no tienen voluntad aquí firmamos un acuerdo todos

qué están haciendo ustedes en relación a ese acuerdo van a pasar de las palabras a los hechos van a poner foronda como una de sus prioridades dejando

como son la construcción del tren de alta velocidad fuera de su agenda política van a priorizar lo que ya existe donde ya hay trabajadores trabajando donde podemos llegar a perder mucho más de lo que perderíamos por la no construcción del tav para el dos mil diecinueve pero es que ustedes solo cumplirían

y lo volverían a hacer como ya lo han hecho con pinosolo como ya lo han hecho

y lo volverían a hacer como siempre que pueda haber dinero público para llenar los bolsillos de sus amigos eskerrik asko

se descalifica usted a sí mismo no entendemos y por supuesto tampoco compartimos el modelo centralizado y exclusivo a favor de la administración del estado de gestión aeroportuaria la competencia aeroportuaria está recogida en el estatuto de gernika y así lo defendemos

similar al de los estados centroeuropeos donde la participación de los gobiernos regionales y las instituciones locales es algo estructural tenemos muy cerca por ejemplo el modelo del aeropuerto de biarritz eso es lo que nosotros defendemos sin perjuicio de ello

como siempre con la voluntad de trabajar en la mejora y desarrollo de la oferta de transporte aéreo también insistimos al ministerio para que atienda las peticiones de la sociedad alavesa y la sociedad vasca y de las instituciones en particular también de este parlamento para impulsar el desarrollo de foronda en la reunión que mantuve

también le planteé la necesidad de adecuar las tasas del horario restringido a las cuantías de las tasas en horario operativo

sí fue atendida y han respondido atendiendo a esta solicitud mediante la modificación legislativa pertinente por tanto y una vez más reitero

un extraordinario potencial que no se puede perder y este gobierno va a seguir trabajando y comprometiéndose con foronda porque es una infraestructura clave para el desarrollo socioeconómico